ilícita blanqueo de capitales fraude en la contratación prevaricación cohecho

malversación continuada de caudales públicos tráfico de influencias etcétera etcétera estos son algunos de los delitos

a entre otros el entonces diputado foral de álava vicepresidente segundo de caja vital y burukide alfredo de miguel

aitor tellería y koldo otxandiano ainhoa bilbao araceli bajo iratxe gaztelu urrutia alfonso arriola iñaki san juan josu arruti jesús arruti aintzane de miguel sergio fernández oleaga prudencio hierro

errazti y unos cuantos más y todos y todas ellas

veintisiete delitos puntuales con veintiséis imputados puntuales el caso de corrupción puntual que hoy puntualmente

al pnv ez da hórrela erkoreka jauna quizá el hecho de que la mayoría de los imputados sean cercanos al señor egibar quizá el hecho de que algunos formasen gobiernos del pnv o quizá que fuesen los máximos dirigentes de este partido en araba

que hoy en este parlamento el pnv vaya a oponerse a que las instituciones dejen de mirar hacia otro lado ante una autentica

gauza bat gogoratzen dizuet esas instituciones son de todos y todas las vascas no son ni de ustedes ni de su partido

lo ha pagado toda la ciudadanía vasca y ustedes como gobierno están obligados a defender los intereses de esa ciudadanía no

pero lo hacen después de que el gobierno vasco personado como parte interesada en la causa no les interrogase para esclarecer los hechos no defendiese la actuación de la ertzaintza en la investigación y no apoyase las peticiones de la fiscalía contra esta gente el abogado del gobierno vasco cuando el juez le daba el turno

acusada de tener prácticas auténticamente mafiosas que tenían tal sentido de impunidad que no les preocupaba usar en sus chantajes el membrete de la diputación que presentaban pruebas falsas que chantajeaban al partido para que no les dejasen solos ha encontrado como ayuda la inoperancia

ha encontrado las palabras constantes de apoyo

son innumerables las veces que usted ha salido públicamente en defensa de los acusados de corrupción marzo de dos mil diez

marzo dos mil dieciséis enero dos mil dieciocho señor egibar va a tener hoy el coraje que no valentía

va a reafirmar en declaraciones como que y citó literalmente son escandalosas las penas pedidas por la fiscalía contra

o que se ha pisoteado su presunción de inocencia o lamentarse los largos años de incriminación pública señor egibar

sé fuerte chicho sé fuerte señor urkullu que no está pero me estará escuchando

no deje también que le hunda ese compromiso ético contra la corrupción del que nos hablaba la semana pasada

está a tiempo de comprometer a su gobierno en la lucha contra la corrupción y en la defensa del interés general

reprobar las declaraciones y actos de apoyo a los imputados por corrupción rechazar la corrupción y el clientelismo que tantísimo daño hacen a euskadi comprometer al gobierno vasco para que deje de ser un espectador en el juicio les pedimos

y que se unan a la fiscalía pidiendo penas contra esta gente en definitiva

porque aún confío en que sea capaz de reconducir la actuación de su partido y de su gobierno esan dezagun argi eta ozenki gure herrialdean

quiere que la ciudadanía vasca pueda sentirse defendida y protegida por su gobierno quiere sentirse orgullosa de que no hay ningún tipo de impunidad con la corrupción esta iniciativa quiere que este gobierno deje de estar callado

hacia otro lado a mí si me roban en casa me presento como acusación y si nos roban en la casa de todos y todas le vuelvo a recordar que las instituciones no son del pnv a este gobierno le toca presentarse como acusación

de butaca fila cero porque hasta ahora es a lo único que se ha dedicado este gobierno a ver y callar y es que la desfachatez

en este caso ha marcado auténticos máximos han callado incluso cuando se vertían

contra la policía que su gobierno dirige nadie de la dirección

que trabajaron en la instrucción del caso nadie de este gobierno salió en defensa de esos agentes ni se desautorizó

del partido nacionalista que al mismo tiempo salió defendiendo la inocencia de sus amigos del pnv

hace unos meses interpelado en este pleno por mi grupo por elkarrekin podemos dijo que les correspondía defender el interés público y que así lo iban a hacer así cómo esperando el veredicto final cruzando los dedos para que

estamos ante un caso en que la impunidad con la que actuaban los miembros de su partido era total era

y en la actitud de este gobierno durante el caso pedían mordidas en el membrete oficial de las instrucciones en las que estaban colocados zergak ere

o chantajeaban directamente a las personas que se negaban a participar en sus corruptelas pedían comisiones por adjudicar contratos a dedo

que han pagado toda la ciudadanía por trabajos que nunca realizaron como los contratos desde la dirección de juventud del departamento de cultura que beneficiaban a tres empresas

errexal y ortzi muga todas ellas vinculadas a la trama de miguel

contratos que se han intentado justificar con documentos plagiados copiando manualmente de una academia de galicia sí han oído bien

no están justificadas no hay constancia documental en los archivos de la administración de que las empresas realizaran los trabajos por lo que sí cobraron

exdirector de juventud del gobierno vasco por supuesto con carnet

informe que justificaba una de las adjudicaciones un documento plagiado que se suponía había desarrollado la empresa errexal

del pnv de leioa y que se suponía era la memoria de un curso que nunca se impartió por cierto

en otra sede documentación aportada aparecen elementos apuntan a falsificación verdad señor erkoreka como los diferentes sellos

que se emplean y que guardan diferencias tipográficas importantes con los presentados y es que la chapuza llega

en esta institución el portavoz del pnv se abrazaba con personas imputadas por chantaje fraude o robo sinceramente nos suena todo plagios cuadernos con apuntes contables el chico sé fuerte del señor egibar en forma de abrazo solo nos falta

señor consejero señorías desde luego nosotros no vamos a hacer una descripción de lo que todo el mundo conoce muchos de ustedes también son testigos de que de esta cuestión debatimos en su día también en este parlamento largo y tendido

esta proposición no de ley tiene que ver con el enjuiciamiento del mayor caso de corrupción

y que afecta de lleno al partido nacionalista vasco y a sus órganos de dirección que fueron personas

en el banquillo por comportamientos delictivos de distintas procedencias e instituciones del gobierno de la diputación de ayuntamientos de parques tecnológicos bueno eso lo sabe todo el mundo

entendemos que la iniciativa que nos plantea el grupo elkarrekin podemos no está bien ubicada ahora en un pleno

como este no está bien ubicada además estando en pleno juicio en la fase final del proceso no en la fase final del juicio yo creo que hoy se desarrolla muy cerca de esta sede un proceso judicial

y entendemos que el provocar hoy este debate con un pronunciamiento de la cámara pues es manifiestamente inoportuno y bastante innecesario no no sé se está juzgando estas actitudes que la señora macazaga

con todas las garantías garantías que algunos ponían en entredicho pero con todas las garantías

oral podíamos haberla debatido también ha estado metida en el cajón para sacarla ahora

para nosotros es el momento de los tribunales y no es el momento de las declaraciones políticas pero en fin habrá que hacerlas porque si se nos obliga es su decisión no la nuestra está claro que la iniciativa se sustenta en una innumerable

de intromisiones de ataques que dirigentes políticos afectados políticamente por este caso han hecho contra jueces contra fiscales contra la instrucción contra la investigación policial

alguno lo ha recordado todos los recordamos no han sido muchos los dirigentes

arremetido contra el proceso en todas sus fases se sentían dolidos y han arremetido es

la práctica política como debe de ser para

de una manera constante en este proceso intolerables criticas al juez instructor a la fiscalía a la investigación policial

rechazado y hemos visto un rosario de todas esas críticas

absurdas un rosario por parte de importantes dirigentes nacionalistas la señora macazaga recordaba algunas del señor egibar que se ha referido en repetidas ocasiones a ello hasta

se ha permitido en diferentes fases la crítica a los protagonistas judiciales de este proceso que hoy

por lo menos a su partido hemos visto abrazos muestras de apoyo

encausado sin preguntas una especie de protagonismo que se le concedía

y además de todas esas cuestiones que hemos visto además esas críticas a la investigación esas críticas injustificadas a la investigación en todas sus fases y hoy estamos en una fase previa a la sentencia y eso podemos decir en esa situación procesal esa fase previa a la sentencia ese juicio tal y como estamos viendo por los medios de comunicación podemos decir que descalifica todas esas actitudes hostiles

eso es lo que está descalificando todas esas intervenciones no tanto el debate que podamos hacer ahora ese juicio y esa fase en la que estamos

con todo lo sucedido en torno a ese caso también conocido como caso kataia

caso y sus derivadas fueron

que se celebró les recuerdo entre los años dos mil diez y dos mil doce y se redactó y aprobó y les aconsejo que el que no

un amplio dictamen con conclusiones con recomendaciones al gobierno sobre comportamientos sobre sistemas de control de la administración sobre responsabilidades políticas en relación con lo sucedido les aconsejo desde luego la lectura de ese

dictamen que aprobó este parlamento en cuarenta sesiones de reunión muchas horas de trabajo vuelvo a decir casi dos años de trabajo parlamentario

trabajó esta comisión de investigación la constatación de responsabilidades políticas ahí están en el dictamen la constatación de perjuicios para la administración pues todo eso supusieron un reproche político y público muy mal encajado por la dirección nacionalista hasta la fecha

eso fue hace unos años hoy lo que queremos de verdad es que el juzgado actúe y se pronuncie que los jueces actúen

y digan lo que deban decir después del análisis judicial de los hechos para nosotros no es bueno contaminar ese trabajo es el momento de la justicia

no hemos sido los autores de la iniciativa pero se nos ha presentado una transacción que lógicamente compartimos en parte ya que alguno de sus párrafos pues es muy similar básicamente

dice que el parlamento vasco reconoce y apoya

como policía judicial y de la fiscalía en sus respectivas labores ante los tribunales y reprueba las declaraciones públicas y pronunciamientos políticos que tratan de entrometerse en las actuaciones judiciales me parece de cajón parece de primero de política de primero de parlamento pero hay que recordarlo

se esforzaron en descalificar a la fiscalía al juez instructor a la policía judicial y a toda la fase previa a este momento en el que vivimos así que

de la enmienda de transacción que nos presenta

está bien claro que el punto número tres donde hablan de que el pleno del parlamento vasco insta al gobierno vasco a mantenerse

no votaremos a favor de ese punto tres el gobierno vasco ha funcionado

en todo el proceso judicial como un estorbo no como un facilitador no coadyuvando con la administración de justicia un estorbo es decir no ha valido para nada es decir está bien claro que no confiamos

esta fase además en este momento esta fase final

seguramente a la sentencia inminente el gobierno vasco es irrelevante

el tribunal están los jueces está la negociación que el fiscal pueda llevar con las partes

lo vuelvo a decir ha sido un estorbo en este momento es irrelevante señora macazaga

iniciativa que vuelvo a decir no es el mejor momento para presentarla muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

y se escucha menos hablar de la primera la corrupción esa que es legal aquella que se ejecuta con ley en la mano y sin riesgo de que el hecho sea tipificado como delito seguramente por un tribunal esa ha supuesto por ejemplo

privatización y externalización de rentables y eficientes servicios públicos y que han servido para financiar en algunos casos incluso partidos políticos o sus fundaciones o colocar a clientela o colocarse

responsabilidades institucionales esa corrupción legal también de la que hablaba esa primera corrupción legal que ha convertido sobrecoste de obras pública en una costumbre también

partidos políticos o los tratos de favor que reciben algunas empresas que ven finalmente sus consejos de administración participados

favor con favor se paga pero lo que hoy aquí debatimos el caso de miguel todo parece indicar que estamos ante un caso de corrupción un caso de corrupción en mayúsculas y con todas las letras de la palabra corrupción corrupción ilegal

es campeón europeo en todas las modalidades de corrupción habidas y por haber seguramente

aurkako fiskaltza bat izatea euskal autonomia erkidegoan es decir en la enmienda a la totalidad que presentaban

partidos políticos que sustentan el gobierno vasco partido nacionalista vasco y partido socialista en el debate parlamentario que tuvimos hace un año sobre la corrupción en euskadi se hablaba de la creación del fiscal delegado para delitos económicos relacionados con la corrupción en euskadi y es verdad también que fue algo que aprobamos todos los partidos de manera unánime pero que a día de hoy no es una realidad

del ejecutivo seguramente el solicitar esto en las negociaciones que mantenido

años con madrid luego teníamos también revisando el acuerdo de gobierno que tienen ustedes señores del partido socialista y del partido nacionalista vasco hablan en cuanto al departamento de seguridad y la ertzaintza hablan en el apartado dosb de formación y adaptación profesional de la ertzaintza hablan de potenciaremos y dotaremos de más recursos

y fiscales y a día de hoy y pasado ya el ecuador de la legislatura no tenemos noticias sobre ello pero además en el ámbito político sino si consultamos la memoria dos mil dieciocho referente al ejercicio dos mil diecisiete de la fiscalía de la comunidad autónoma del país vasco ahí podemos leer en los delitos contra la administración pública interesantes conclusiones

estos delitos son puestos en conocimiento por órganos fiscalizadores como son el tribunal de cuentas o particulares y muy pocas veces por la propia administración afectada y esto por qué ocurre

un esfuerzo de preparación puesto que posibles testigos bien por ser también funcionarios bien por no apreciar ventaja alguna en exponer la irregularidad no suelen colaborar especialmente

añade sigue siendo muy escasa la cifra de denuncias de prácticas corruptas pudiendo deberse al coste personal y profesional que un procedimiento penal supone para

el contrato que está con la empresa stoa que es una de las causas y piezas claves

y parte de responsabilidad es también de este gobierno vasco que es en un sesenta y cuatro por ciento partícipe del parque tecnológico de miñano y es verdad que seguramente en términos legales se pueda mantener ese contrato en vigor pero en términos morales y en lo que con eso se traslada a la ciudadanía

no se está siendo implacable con prácticas que pueden suponer

higiene demokratikoa behar dugu siempre hemos trabajado y seguiremos haciéndolo porque tenemos muy claro que no podemos permitir en la sociedad vasca se instale

o los tratos de favor sean algo normal se perciban como algo habitual no podemos permitir que por ser el hecho

se piense que se puedan obtener ventajas en concesión de subvenciones en contratos en licitaciones o acceso a determinados puestos de trabajo de la función pública eso no es normal y no podemos aceptarlo sin más como si fuese algo normal

y por eso creemos y aludo al primer punto por lo menos que parece ser que el partido popular

creemos que el parlamento debe expresar una denuncia contundente ante quienes pretenden generar dudas sobre la instrucción en el conocido caso de miguel y que

presidenta bien nosotros como grupo socialista

dos legislaturas y lo que trabajamos los grupos en torno a denuncias

rechazo absoluto a cualquier forma de corrupción y clientelismo el rechazo a los obstáculos en las investigaciones y el respaldo a las recomendaciones para garantizar limpieza y transparencia

de estos ciento cincuenta y siete folios de aquella comisión de investigación que se hizo de forma muy eficaz aunque ustedes no estuvieran ya lo siento pero es así y esto fue un trabajo labrado por la inmensa mayoría de esta cámara

en los que entre otras cosas tuvimos también que evitar interferir en lo que de forma paralela avanzaba ya el juez instructor

a la separación de poderes y tratamos de hilar fino bajo la dirección en aquel momento del representante de eusko alkartasuna

y el grupo socialista situamos allí con claridad cuál era el ámbito y el límite en cuanto al señalamiento de responsabilidades políticas y de responsabilidades propias de las administraciones para evitar nuevos casos y lo hicimos en el caso de miguel en el de margüello en el de hiriko después y lo hicimos también

cuando desde el gobierno se comunicaron las irregularidades a quien correspondía por no dejar uno solo de los asuntos que elkarrekin podemos ha decidido resucitar ahora al parecer pues quizás porque ellos no estuvieron en su momento

esta semana no respecto a la enmienda que han pactado ustedes con bildu pues he de reconocer que me sorprende positivamente

es una novedad pero una novedad positiva que hasta ahora no habíamos observado aquí y en estas ciento cincuenta y siete páginas se da cumplida cuenta de todos los trabajos en las cuatro líneas de investigación abiertas que explica la plena colaboración

en toda la instrucción judicial y que en el caso concreto del que viene esta iniciativa dice expresamente no compete a este parlamento determinar si su actuación en relación con los contratos investigados en este parlamento merece reproche penal

en las irregularidades he comenzado diciendo que los socialistas nos ratificamos en ese dictamen también en este punto que acabo de leer y es pertinente porque estamos justo en el momento que esperábamos en el de que establezcan y depuren

de quienes han accedido a todas las pruebas a todos los documentos a todos los testimonios gracias al trabajo de los investigadores y a la colaboración del gobierno de entonces por tanto reconocemos expresamente el ingente trabajo realizado por la fiscalía

y reconocemos el ingente trabajo desarrollado por supuesto por el juez instructor

la iniciativa que debatimos hoy todo esto señora macazaga está ya en manos de un tribunal donde los acusados han tenido y tienen el derecho a ejercer su defensa

y en uno y otro caso será el tribunal y solo el tribunal el que determine las penas esta es la posición que debemos dejar clara aquí salvo que alguien igual de retracte de lo que avaló hace seis años que incluye el párrafo que he citado

desprecie el trabajo que tanto tiempo nos ocupó en aquel momento los socialista no sentimos especialmente satisfechos por aquella tarea que contribuyó por cierto a la apertura del procedimiento judicial porque aquella legislatura que tuvimos en la que tuvimos el honor de abrir un nuevo tiempo en euskadi

pusimos en pie también prácticas políticas e institucionales que parecían imposibles en aquel momento por recordar alguna hace dos legislaturas en euskadi se inició una experiencia

el primer código ético y ahí se establecían las obligaciones de comportamiento de todas aquellas personas que asumían

a ello se añadió una web abierta de información irekia que servía y sirve para dar cauce a la participación ciudadana permitía y permite interesarse directamente por cada asunto

también se publicitaron las condiciones para la contratación pública el perfil del contratante se abrieron los datos en manos del gobierno para su reutilización pública como open data

euskadi logró la máxima puntuación de transparencia internacional hoy en esta cámara se está trabajando una ley que no pretende una mera reordenación de esas buenas prácticas sino que busca que se pueda seguir el rastro de cada euro que los ciudadanos dejan en manos de las administraciones

vuelve al propio ciudadano sea en forma de prestación de servicios de ayudas diversas o de becas por ejemplo

pero es evidente que aquello que empezamos a construir está dando frutos y una vez que este parlamento hizo el trabajo que le correspondía

una vez que se colabora con la justicia una vez que esta está en proceso de establecer las responsabilidades penales los socialistas consideramos que hemos contribuido de forma clara a que las cosas sean como deben ser compromiso de colaboración con los investigadores compromiso de dar un vuelto a las prácticas de contratación desde el sector público

a la separación de poderes que es de lo que habla la enmienda transada con el pnv y nos gustará más o menos lo que decidan los tribunales podrán satisfacer las expectativas pero nosotros vamos a respetar sus tiempos y este tiempo el de hoy veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho en el que ustedes han decidido rescatar esta proposición

y seguir volcados en mejorar la transparencia de nuestro sector público es lo que buscamos hace seis años y es lo que nuevamente reiteramos ahora

azaltzen duen bezala consecuentemente manifiesta su respeto a los tiempos judiciales y a las resoluciones y sentencias que puedan dictar los tribunales de justicia

en nombre de todos los parlamentarios luego no hay duda

señor pastor tengo que recordarle que sí estábamos miren venir hoy aquí con una enmienda que habla de separación

de poderes es cuanto menos para reír un juez sentencia cuando el interesado la parte afectada pide una condena

no pide pena pues el juez lo tiene más difícil todo queda en manos de la fiscalía la acusación la parte interesada en este caso el gobierno vasco

pero tiene que pedir penas para que el poder judicial sí pueda condenar sinceramente

mejor vuelvan a la estrategia de sacarse fotos con los acusados y decir en su inocencia que no su presunción de inocencia que es en la que creemos todos en esta cámara a preguntas de mi grupo

estamos cerca de conocerla aunque puede que con autoinculpaciones negociadas

está el señor urkullu en condiciones de decirnos qué acciones tomará su gobierno

de que esto ocurra señores del pnv

que pueda autoinculparse como corrupta está en condiciones de representarles

señor egibar es usted consciente de que hoy esta cámara el parlamento vasco

si reprobar sus declaraciones y actuaciones de estos años sobre una trama corrupta entiendo sus cautelas

la largada sombra de la corrupción hoy primer pleno del nuevo curso político primera derrota parlamentaria del gobierno y con un caso

gracias a la oposición gracias a la transacción con eh bildu y gracias al partido popular

era de justicia señalar las vergüenzas del gobierno y muy particularmente del partido nacionalista vasco en este caso de corrupción

eskerrik asko berriz ere legebiltzar buru andrea el señor pastor hablaba de las conclusiones de la comisión de investigación

y es verdad hay que tenerlas en cuenta y yo por lo menos las conclusiones las tengo leídas y también tengo leída la posición que los determinado partidos políticos tuvieron

para saber que el partido nacionalista vasco aquellas conclusiones las tildó cuanto menos de caza de brujas y hoy

se está conociendo se está viendo por cómo está el proceso judicial pues bueno que aquellas conclusiones

creo que el pnv en este sentido respetó aquellas

en el seno de la comisión de investigación decía también el señor pastor que es una novedad que nosotros de alguna manera valoremos positivamente

no se confunda no somos sectarios nosotros a veces valoraremos positivamente la labor de la ertzaintza y otras veces no nos gustará tanto

si hacer justicia y si de aclarar en este caso casos de corrupción se trata como si tenemos que acudir al papa y a la santa sede

sin más no me parece tampoco que sea lo llamativo o subrayable en la iniciativa y en la transaccional que hemos firmado con el grupo de elkarrekin

ayer tuvimos la ocasión de escuchar también en esta cámara a la

y hablaba de la dificultad de la detección de los casos de corrupción y hablaba que solo se detectaban un diez por ciento de casos de corrupción y esto por qué ocurre pues como he dicho antes porque no hay medios suficientes no hay medidas suficientes para la detección de estos casos de corrupción y por lo tanto ese puede ser uno de los motivos y lo

para que no conozcamos a día de hoy en araba bizkaia y gipuzkoa más casos de corrupción y por eso

que parece que pueden tener hasta ciertos tintes de ser estructurales y unas

cuanto menos rechazables pues no sabemos si son solamente la punta

o sabemos y podemos pensar que es una punta del iceberg pero no sabemos si ese iceberg cuanto de profundo y de grande es

dicho derecho de presunción de inocencia pero es que resulta que en la fase procesal en la que estamos del juicio de miguel

lo que están negociando son sus penas son sus penas por lo tanto de alguna manera en ese momento en el que tú entras en un

la culpabilidad parece ser que está asumida eta handitzen zarenean ikusiko duzu isilik egotea zenbat balio duen

egon ziren horretan y es que podemos leer en esa intencionalidad de poner en duda el propio proceso judicial y es uno

y que había sobradas muestras de excesos en la justicia española o criticaba también el partido nacionalista vasco que el juez haya empleado párrafos de copy paste de la comisión de investigación que antes he mencionado y se dio en el seno de este parlamento o

a las puertas de las elecciones autonómicas perdón municipales y forales de dos mil quince

o cuando ortuzar habla y cito textualmente de maltrato al pnv con el caso de miguel

que afirma que en el caso no se han dado todas las garantías procesales entonces lo que no me vale es

en algunos determinados momentos a determinadas formaciones políticas cuando uno en otros determinados momentos no ha querido guardar ese silencio y

de intentar irrumpir en el propio proceso judicial eskerrik asko estarrona jauna

bueno brevemente porque creo que las posiciones están muy claras nosotros lo que no queremos caer

en el adanismo traer aquí una propuesta como hace podemos dando la impresión de que este parlamento nunca ha trabajado sobre esos temas

aquí ha habido un trabajo muy serio de año y medio durante mucha gente y ustedes me reafirmo señora macazaga no estaban

en elkarrekin podemos pero no elkarrekin podemos no vamos a contar medias verdades

respecto de la ertzaintza yo me reafirmo en que me alegro me hubiera gustado más que hubieran firmado un apoyo expreso a la ertzaintza como se recogía por cierto en la propuesta original eso no han querido hacer han cambiado un poquito la redacción pero en fin

y por lo demás yo quiero volver a insistir en poner en valor el trabajo que se hizo

de hace dos legislaturas que fue serio y consistente y que además ha ayudado al trabajo de la justicia y ahora estamos en otro tiempo distinto el de los jueces que por cierto están a punto de terminar su trabajo y espero que lo hagan bien usted se refería al pnv y al señor egibar y no es mi función ni mi estilo

cada cual es dueño de sus palabras y de sus silencios pero sí de poner en valor lo que este parlamento esta cámara en la que estamos ha hecho que desde luego no ha sido ni negligente

los primeros los socialistas y ese sigue siendo nuestro espíritu y ahora les toca a los jueces

que estimen más convenientes y creo que esa es ahora la parte que nos toca

gracias señora presidenta señorías señores consejeros señora consejera señor lehendakari que no le había visto decíamos en la interpelación que desde el grupo

e infraestructuras señora tapia referente al sector agroalimentario vasco y la contribución eficiente que hace tanto al a agenda dos mil treinta y los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible que se

metas decíamos que el sector agroalimentario es básico el acceso a la alimentación de la población y por lo tanto es un sector empresarial con implicaciones directas en el bienestar y la salud de los consumidores también tiene implicaciones en el trabajo y en las condiciones de vida de millónes de personas y sobre los recursos de planeta dependiendo del modo y manera que utilicemos en las producciones

cuando hablamos de sector agroalimentario nos referimos

esto que se dice muy rápido tiene implicaciones en cada uno como les decía de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible y en cada una de las ciento sesenta y nueve metas cuando hablamos de sostenibilidad desde la óptica social económica y medioambiental si además hablamos de sector agroalimentario tenemos que tener en cuenta cada vez más que el consumidor el cliente basa su decisión de compra en cuestiones de salud y seguridad alimentaria nos

autónoma vasca nosotros como grupo

y por eso desde la moción que nosotros presentamos hacemos referencia en el punto uno a esas aportaciones y decíamos que en el contexto del plan estratégico

dos mil diecisiete dos mil veinte queremos o creemos necesario que se realice un análisis nosotros decíamos anexo en la enmienda de transacción lo hemos denominado análisis de la contribución del sector agroalimentario a los objetivos de desarrollo sostenible

agroalimentario de euskadi y proponga las claves para ir superándolos e ir avanzando también

la agenda dos mil treinta y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible como una obligación no como una opción y las administraciones tenemos el papel

y la obligación de transmitir esto a los diferentes sectores implicados

debe ser un apoyo una colaboración para un pleno

y en eso hemos basado nuestro punto número dos y número tres de la moción además a esta moción se han hecho enmiendas tanto desde el grupo

nacionalistas vascos y socialistas vascos y también desde el grupo podemos

yo creo que todos queremos llegar al mismo objetivo que nuestro sector agroalimentario ponga en valor el trabajo que desarrolla y que va a desarrollar en cumplimiento

respetuoso con el medio ambiente para conseguir la agenda dos mil treinta y también estos objetivos de desarrollo sostenible creemos que es importante ponerlo en valor y que poco a poco vaya incorporándolo

que el cliente el consumidor lo vaya conociendo y sea valor añadido para los productos que ponemos a la venta por eso en la iniciativa en la enmienda de transacción que hemos

como les decía hemos incorporado el punto número uno del grupo popular de la moción también dos puntos del grupo nacionalistas vascos y socialistas vascos y también otro punto que recoge la enmienda de

elkarrekin podemos lo que venimos a decir es que además

ámbito de una memoria del impacto esperado sobre el cumplimiento de la agenda dos mil treinta conforme a lo establecido en la agenda euskadi

dos mil treinta que también se debe elaborar un informe anual de seguimiento de las actuaciones desarrolladas en el marco de la cadena de valor de la alimentación y gastronomía vinculadas con los objetivos y metas establecidos en la agenda dos mil treinta

que se debe realizare un trabajo colaborativo junto con el sector agroalimentario y en particular con el clúster de la alimentación para la elaboración

eslabones de la cadena agroalimentaria a diseñar acciones para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible

y minimizar el impacto ambiental sobre el entorno todo ello teniendo en cuenta los principios de economía circular además creemos que hay que divulgar la agenda dos mil treinta sus objetivos y las metas que de ello se derivan tanto a los agentes y a las empresas de los tres

con el objeto de trabajar en la superación de los retos a nivel local para contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel global y el parlamento vasco insta al gobierno vasco y al resto de instituciones vascas a que en el marco del programa de compra y contratación pública verde del país vasco dos mil veinte priorice la contratación de aquellos agentes del sector agroalimentario vasco que acrediten una mayor contribución al cumplimiento de los objetivos de desarrollo en su actividad dentro y fuera de euskadi en definitiva hemos llegado a este acuerdo que creemos que es identificar aquellas

cómo vamos cumpliendo estos objetivos y dónde tenemos que centrar los esfuerzos para conseguir los objetivos que nos plantea la agenda dos mil treinta y como hemos llegado a este gran consenso entre todos no tengo nada más que decir agradecer a los grupos

que han tenido para llegar a esta enmienda de transacción que nos parece importante y bueno cada uno

estos temas de ir evaluando cómo vamos avanzando y trabajar en que la agenda dos mil treinta los objetivos de desarrollo sostenible sean ya formen parte de la actividad agrícola de la actividad del sector primario agroalimentaria en la producción en la industria en la transformación y en la distribución

somos lo que comemos y si somos lo que comemos podríamos decir que euskadi es una sociedad insostenible que derrocha agua y energía

si somos lo que comemos euskadi es una sociedad que promueve la pobreza la miseria la desigualdad y la precariedad laboral en otros países y si somos lo que comemos

destruye los bosques y desertifica las tierras de cultivo pero yo no creo que euskadi sea así sinceramente no lo creo ahora bien

las sociedades civilizadas las sociedades modernas y euskadi entre ellas es un sistema alimentario injusto insostenible e insolidario

elikadura subiranotasuna ese es nuestro reto

qué sistema alimentario queremos y en eso consiste la soberanía alimentaria en decidir si queremos que nuestro sistema alimentario sea justo o injusto sostenible

o insolidario y decidiendo qué tipo de sistema alimentario queremos decidiremos qué tipo de sociedad queremos construir también y aquí tengo que decir que euskadi ha decidido apostar por el desarrollo sostenible no solamente ha decidido apostar por el desarrollo sostenible sino que lo ha escrito lo ha escrito en la agenda vasca dos mil treinta de desarrollo de los objetivos

por lo tanto lo que nos corresponde es analizar cómo está funcionando nuestro sistema a día de hoy y cómo se comportan los diferentes agentes están integrados en el plan de alimentación y gastronomía vasca dos mil diecisiete dos mil veinte porque si de verdad promovemos un desarrollo sostenible si como sociedad estamos en contra de la pobreza estamos en contra del hambre a favor de la paz de la justicia de la igualdad del bienestar

del desarrollo económico responsable entonces tenemos que conocer cómo está funcionando nuestro sistema alimentario y no va a ser fácil no va a ser fácil determinar cuáles son los impactos de nuestro sistema alimentario

en euskadi se importan y sin embargo el plan vasco de gastronomía y alimentación hace referencia a lo que producimos aquí a lo que producimos aquí al diez por ciento sin embargo del resto del otro noventa por ciento no hay noticias

no hace ninguna referencia a ello está dirigido a vender más en el exterior a exportar pero no se preocupa de lo que importamos el plan de acción exterior busca vender nuestra imagen pero no se preocupa de lo que hacen nuestras empresas en el extranjero la agenda vasca que ya he mencionado de desarrollo sostenible que está centrada

se preocupa de cómo actuamos en el exterior para traer los alimentos que necesitamos ez da erraza izango beraz baina

gure elikadura sistema zein eragin txarrak dituen tenemos que conocerlos para luego poder actuar

es insostenible por qué los alimentos se llevan el ochenta por ciento del agua potable del planeta por qué una hamburguesa necesita dos mil quinientos litros para poder producirse por qué un tomate necesita

y por qué esos ochenta litros de agua que necesita un tomate no son los mismos cuando se produce aquí en euskadi que cuando se produce en almería por qué los alimentos kilométricos provocan una cuarta parte del cambio climático en mil novecientos noventa y dos

analizo cuántos kilómetros habían recorrido los ingredientes de un yogur de fresa

cada día en españa se exportan tres mil quinientos cerdos vivos

y estoy hablando solamente de la especie porcina pero además nuestro

y voy a poner solo tres ejemplos para ilustrarlo tres alimentos que consumimos habitualmente el salmón los plátanos y el pollo

nuestros arrantzales tienen dificultades a veces para vender el pescado el pescado que pescan los peces que pescan en el cantábrico

el salmón es un alimento cotidiano lo traemos de muchos sitios por ejemplo de chile en chile la región que más salmón produce

acumula el veintidós por ciento de la pobreza en su población los plátanos

en concreto las bananas no en vano se habla de repúblicas bananeras dos empresas tienen del negocio mundial de bananas una de ellas chiquita consta en los archivos de los servicios secretos norteamericanos por haber financiado los paramilitares de colombia más

y en toda centroamérica los sueldos de quienes producen la banana no son

jornadas de diez a doce diarias de diez a doce horas diarias mujeres que ganan entre tres y cuatro veces menos que tienen que acostarse con los supervisores para poder mantener el trabajo eso es la realidad cotidiana del cultivo de banana que no del plátano de canarias

se produce por apenas diez grupos empresariales uno de ellos tiene el veinticinco por ciento

nutreco es el propietario de ese grupo

es de nutreco la variedad genética de pollitos que tienen en las granjas

es de nutreco los veterinarios y veterinarias nutreco controla las granjas de engorde y son de nutreco los mataderos y las salas de despiece se me olvidaba decir que nutreco a pesar de ser una compañía holandesa

esta es la realidad de nuestro sistema alimentario por eso tenemos que conocer para poder actuar eta ezagutzak ez du ezertarako balio

planteamos necesitamos activar necesitamos reactivar la compra pública verde como

tractor de una forma nueva de alimentarnos y lo necesitamos para impulsar y apoyar a las empresas que mejor lo estén haciendo si creemos realmente
en un desarrollo sostenible si creemos realmente que otro mundo es posible pongámonos en marcha eskerrik asko becerra jauna

presidenta señorías desde la hora en la que se ha iniciado hoy

esta sesión del parlamento ha nacido cuarenta mil personas en el mundo

la agenda dos mil treinta es una agenda de obligado cumplimiento yo añadiría que

es la única solución para salvar el planeta porque las perspectivas hoy hablamos de un sector

pero las perspectivas de la humanidad de no poner remedio y de no seguir

dos mil treinta auguran una paulatina autodestrucción del planeta y de todo lo que en él alberga por lo tanto estamos ante un asunto de máxima actualidad pero también de máxima responsabilidad

ocariz es una iniciativa que conviene no solamente observar sino apuntarla también como

no solo de este objetivo sino de los diecisiete objetivos de esa agenda dos mil treinta porque este parlamento no estará trabajando en balde

y cuantas más decisiones tome en relación al cumplimiento de esos objetivos de la agenda dos mil treinta es evidente que

de debate y este está muy bien tiene una parte de concreción de acuerdo como el de hoy y también está muy bien y ya tiene una parte que es magnífica y es de ejecución de esos acuerdos de esas políticas y que además son

central de la política porque de nada servirían los pronunciamientos de este parlamento

medidas presupuestarias para que políticamente se lleven a la práctica hace unos meses tuvimos la oportunidad una delegación de este parlamento

y allí intercambiamos impresiones con muchos países y con muchas organizaciones que estaban también hablando de estos asuntos aunque en aquel caso en ese momento se hablaba más del empoderamiento de la mujer y de la atención a la mujer rural y cuando

impresiones entre distintas delegaciones yo siempre que algún país decía que parte de sus objetivos ya estaban contemplados en el futuro de las acciones políticas de sus países les preguntaba y cuánto hay en los presupuestos porque yo creo que es ahí donde hay que perseverar

también la política presupuestaria se convierte

y que por lo tanto en los próximos meses también deberemos de tener una atención a que esto sea así a que las políticas presupuestarias acompañen a los pronunciamientos políticos y a los grandes objetivos que tiene la política

que al igual que pasa con los pronunciamientos políticos sea colectiva que sea del conjunto de las fuerzas políticas de esta cámara porque de otra forma no sería posible

propuesta transaccional de todos los grupos es un pronunciamiento razonable

de potenciar a las empresas que trabajen en la eficiencia y que trabajen

las materias naturales que son finitas del agua de la generación

de la calidad de la alimentación que también traten de obtener el máximo aprovechamiento que cumplan los objetivos fundamentales que tiene la alimentación que no son los de producir mediante la avaricia grandes fortunas y riquezas a las grandes cadenas de alimentación sostener a la población sabiendo que además la alimentación es un elemento decisivo para la salud y por lo tanto también para espacio de vida en el que estemos en este mundo se plantea en esa enmienda transaccional que haya una actuación intergrupos que se relacione también

con los sectores que están concernidos en el campo de la alimentación y por lo tanto

esto no sale solo de la política sino que esto sale adelante si hay una colaboración amplia y directamente implicados esos sectores que producen los alimentos y que tienen que vigilar también por su calidad por su sostenibilidad en fin por todas las cosas que ya se han dicho aquí

divulgativa y de seguimiento divulgativa de los objetivos de seguimiento en cuanto a los resultados en fin yo creo que la enmienda transaccional

presentó la proponente cuando hizo la iniciativa y que eleva a este parlamento a un compromiso total

sabiendo que en las evaluaciones que se están haciendo no tanto en euskadi pero en general en estos momentos los países estamos todavía muy lejos de los compromisos que hemos adquirido en europa salvo

de estar en la buena senda del cumplimiento de los objetivos por lo tanto hay que acelerar hay que imprimir velocidad y

en esa dirección pues esta iniciativa busca también

y mediante el compromiso situar en la agenda política de cada día y de este parlamento en su escala en la medida

sus competencias que vayamos llegando al mismo por lo tanto nada más que señalar y creer que es una buena

que nos homologan

del conjunto de la ciudadanía pues podamos hacer expresiones
unitarias como la de hoy muchas gracias eskerrik asko prieto jauna

dena birpentsatu beharrean gaude la señora lópez de ocariz nos trae hoy el debate de la agenda dos mil treinta en lo referente al sector agrícola

y su propuesta es bienvenida todos los sectores deben involucrarse en la consecución de estos diecisiete objetivos por supuesto también el agroalimentario

integrando las políticas de sostenibilidad ahí están por citar alguno el plan de alimentación saludable o el plan estratégico

las empresas del mundo se están uniendo en un pacto global auspiciado por naciones unidas que en este momento

de las cuales más de cien son vascas también algunas de ellas pertenecen al sector agroalimentario dentro de esas más de cien empresas vascas adheridas

y nos parece pertinente que además de esas alianzas promovidas desde naciones unidas

entre los agentes de cada sector para ir conformando las piezas que nos ayuden a construir la sostenibilidad el lunes en la presentación de artium nos hablaban de tejer

en el que cada pieza debe ser perfecta perfectamente diseñada con sus funciones perfectamente acotadas pero que además es capaz de ensamblarse con el resto de piezas para construir una estructura sólida estable y duradera

los planos de la estructura pero nos corresponde a cada uno de nosotros y nosotras trabajar las piezas que están a nuestro alcance para así contribuir a esa construcción colectiva no esperemos recetas no las hay tenemos que hacer camino al andar solemos decir que para ir rápido hay que ir solo pero para ir lejos hay que ir acompañado por eso valoramos hoy

en esta iniciativa en la transacción que aprobaremos hoy como digo por unanimidad ponemos el foco en el sector agroalimentario y en la medición

y transparencia de sus políticas y acciones y creemos que la iniciativa es válida y oportuna todavía mejor una vez mejorada con las contribuciones de los grupos pero sobre todo creemos que lo que realmente tiene importancia es el acuerdo la capacidad para lanzar un mensaje claro

por el futuro de nuestra especie y mostrar nuestra determinación la de todos y todas a poner todo lo que esté en nuestras manos para llevar a cabo esta necesaria revolución mila esker

y ya es hora de pasar de ese desarrollo austericida

sectores estratégicos en el centro y avanzar hacia un planeta sostenible para todos y para todas ezin dugu politika

y que todo salga bien ya va siendo hora de que nos arriesguemos de que cambiemos el rumbo de nuestras políticas y empecemos
a sostener la vida de todos y todas eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta anderea erantzunen txandara pasatuz

y confía en su pronta reanudación de diálogos con el gobierno

celebramos la liberación de las seis personas que se encontraban en poder

y esperamos una pronta reanudación de los diálogos entre este grupo armado y el gobierno ya que estos permitirán un mejor vivir

esperamos también que en algún momento de los diálogos se llegue a un acuerdo sobre un cese

también felicitamos a la comisión humanitaria por su trabajo en la liberación de estas seis personas a su vez recordamos que el derecho internacional humanitario prohíbe la toma de rehenes tomar rehenes causa profundo dolor y provoca consecuencias difíciles de sanar

finalmente saludamos la voluntad mostrada por el presidente del gobierno español pedro sánchez

a los diferentes organismos internacionales involucrados hasta ahora que sigan promoviendo tanto los acuerdos como los pasos para la implementación y asimismo mostramos nuestra plena disposición